arratsalde on me gustaría empezar haciendo un breve resumen de todo lo que ha sido el proceso

iradier arena en el año dos mil cuatro

una plaza de toros a la altura de un alcalde trepa y con suficientes ínfulas como para dedicarse asimismo una vuelta al ruedo aquellos locos años

de los precios de la vivienda y del suelo alentada por las políticas especulativas del gobierno del partido popular en el estado español ayudaba a que alcaldes amigos del ladrillo pero más de los constructores

carreteras sin coches trenes de alta velocidad sin viajeros y plazas de toros para adorno del centro de la ciudad gasteizko zezen plazaren proiektua hasiera hasieratik

hain zuzen ere alfonso alonso por aquel entonces ejercía de alcalde de gasteiz buscando salidas laborables más propicias para su futuro

y la especulación en la liberalización del terreno de la anterior plaza de toros

sino que encima daría un nuevo uso y rehabilitaría el barrio dándole una centralidad para los y las comerciantes y para los y las vecinas aquella ilusión se desvaneció pronto y desde el inicio ciertos grupos de la oposición del ayuntamiento de gasteiz empezaron a advertir del coste real de tal macro estructura a la ciudadanía

por supuesto nadie les escuchó por lo menos nadie desde la anterior alcaldía en dos mil seis se pone en marcha la nueva plaza de toros

las obras acaban costando más de trece millónes de euros casi nada

ya que el espíritu torero de gasteiz no aparece por ninguna parte se ve que tal inversión no reportará ningún tipo de beneficio social para la ciudadanía al contrario

en ese momento y viendo que tal inversión puede convertirse en un problema político aparece en escena el concepto del multiusos zezen plaza bat erabilera

por todo ello hablamos de un pelotazo para los constructores pagado con dinero público y que aún no hemos

en este contexto de política del ladrillazo y del pelotazo especulativo es donde reaparece el espacio multiusos

hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al responsable político máximo del ayuntamiento de gasteiz tenemos la suerte de tener al máximo responsable del tasazo del iradier arena

han aplicado descuentos de manera discriminada a siete promotoras privadas casualmente de madrid dichas promotoras han cobrado entrada para los espectáculos

a la normativa vigente aun así se las concedieron aun sabiendo que no se ajustaba derecho así lo han reconocido ya y así mismo lo investiga un juez por posible delito de prevaricación habiendo imputado a la ex concejala de cultura

a las bonificaciones que se conceden a las actividades sin ánimo de lucro o de interés social las cuales pueden llegar a optar a descuentos

cobrando entradas por los espectáculos han obtenido descuentos en las tasas de más de un noventa por ciento es esto legal un juez lo dictaminará

normalmente en cualquier ayuntamiento las tasas pasan por la concejalía de hacienda en gasteiz no las tasas pasaban por cultura ahí se negociaban por supuesto con el visto bueno del señor alcalde y por supuesto con el visto bueno

y no podría ser de otra manera en nuestra ciudad también ocurren cosas tan extrañas como que las tasas puedan ser negociadas así lo afirmó el señor concejal de hacienda

por actos similares existían tasas y descuentos diferentes por supuesto el baremo podría marcarlo el nivel de amiguismo

y el partido popular así citando palabras del señor concejal de hacienda la tasa se ha corregido para adaptarla a la realidad

y se atreve a decir a su vez que y cito sus palabras no nos llevemos a engaños si no hay nadie que venga porque los precios son muy caros cobraríamos aún menos

ondorioak ditu herritarren poltsikoetan ustedes conocen a algún representante público que se atreva a negociar las tasas municipales de manera individual ustedes conocen algún representante público que pudiese llegar a decir que mientras la ciudadanía tiene la obligación de pagar las tasas fijadas por el ayuntamiento las empresas pueden negociarlas para que sus beneficios sean mayores

conocen amiguismo semejante y alguien que se ría tanto y tan alto a la cara de la gente

el señor maroto consistió de manera consciente este tipo de actividades

que es usted también tan culpable como la concejala de cultura y de hacienda ríase políticamente

así tanto el concejal de hacienda como el señor alcalde aquí presente pasaban de puntillas por este caso de amiguismo tan fragante

lo que ustedes han pretendido con su actuación es vendernos ese fiasco como un multiusos que acoge espectáculos y eventos varios

y esto se lo digo yo señor alcalde y ya que se ponían a tapar fiascos con dinero público podían a su vez ayudar a sus amigos promotores

y por favor no se atreva a decirme que con esos fiascos se generó actividad económica en la zona no me diga que es el revulsivo para el comercio local

a alguien más que a aquellos que dejaron de pagar lo que debían a la ciudad de gasteiz paso a leer la propuesta que hemos llegado a transar con el partido nacionalista vasco punto primero el parlamento vasco insta al tribunal vasco de cuentas públicas a que realice la fiscalización y el examen jurídico de la ordenanza fiscal y la aplicación de la tasa siete punto once punto tres

de todas las actuaciones que se han realizado en el edificio municipal multiusos en los ejercicios de dos mil ocho a dos mil trece ambos incluidos punto dos el parlamento vasco

la fiscalización de la tasa siete punto once punto tres en el trabajo en curso que tiene abierto sobre el ayuntamiento de vitoria gasteiz para el año dos mil once incorporando al mismo las recomendaciones

punto tres el parlamento vasco insta al ayuntamiento de vitoria gasteiz para que ponga a disposición del tribunal vasco de cuentas públicas los expedientes relativos

al dos mil trece así como los informes elaborados por la secretaría general del pleno referentes a estas tasas esta es la propuesta que hemos transado con el pnv la misma que se votó en el ayuntamiento de gasteiz o por lo menos

la misma que exige que el tribunal de cuentas revise los tasazos del iradier arena la misma que por respeto a la ciudad de gasteiz deberían votar todos y todas ustedes
la misma que posibilitará pedir responsabilidades políticas a aquellos que la consintieron las penales el juez las dictará eskerrik asko

gracias señora presidenta iba a intervenir desde el micrófono pero como al señor lópez de munain le gusta jugar a concejal

seguirle un poco el juego en primer lugar para poner de manifiesto que usted no se entera de nada

los del ayuntamiento pero bastante mal en primer lugar porque

no ha costado ni un solo euro al ayuntamiento de vitoria ni un solo euro al ayuntamiento de vitoria

después de venir aquí y soltar toda esta cosa de los números ni un solo euro sabe por qué

que esa operación no costase ni un solo euro a las arcas públicas ni un solo euro a las arcas públicas

en segundo lugar las

se hacen siguiendo escrupulosamente lo que dicta la ordenanza y cuando en alguna cuestión se pone de manifiesto como en esta

se separan en algún punto como ha sucedido en este caso y se ha hecho público lo que se hace inmediatamente es corregirlo su intervención llega tarde por muchas razones entre otras

entre otras cosas por eso entre otras cosas llega tarde porque el tribunal vasco de cuentas ya está haciendo el informe no hace falta que venga usted a pedir aquí nada

aquí es lo que bildu ha votado con el pp en vitoria y con el pnv también ya ve qué lejos está usted de la realidad

y qué difícil es pasar el trago eso le pasa por jugar a concejal de donde no es y no me extraña que no esté ahí porque hay que hacerlo mejor

poner de manifiesto una cuestión también importante y es que cuando uno realiza una actuación y los servicios técnicos o un tribunal o cualquier equipo técnico pone de manifiesto que una actuación es mejorable lo que hay que hacer es primero reconocer que es así

y es lo que se ha hecho en el acuerdo que está suscrito en el pleno del ayuntamiento de vitoria del que hay réplica

se pide precisamente que se analice la actuación en este asunto desde el año dos mil ocho hasta el día de hoy precisamente para comprobar que las cosas se hayan hecho bien y si en algún momento en alguna cuestión esas

hay un procedimiento que es mejorable hay que corregirlo de forma inmediata como se ha hecho en esta ocasión y continuar con un objetivo

las cosas que ha dicho que es darle potencialidad a un espacio en el centro de vitoria

una potencialidad que requiere además el sector del comercio y de hostelería de la zona

evidentemente con intervenciones como la suya es francamente difícil que un objetivo así se pueda llevar a cabo pero ya sabemos lo que pasa donde gobiernan ustedes lo dicen hasta los propios concejales de bildu de vitoria

entre otras cosas porque de la parálisis de cómo se gestiona cualquier equipamiento allí a cualquier municipio no gobernado por bildu pues es como la noche y el día pero de eso se aprende cuando uno está allí cuando uno está

tan mala como la suya llena de erratas como la suya

es perder el tiempo perder el tiempo usted y a los demás

gracias presidenta buenas tardes vista la propuesta

presentadas parece que todos estamos de acuerdo en que es necesario que el tribunal vasco de cuentas públicas fiscalice la aplicación de la ordenanza fiscal siete punto once punto tres es decir

arena de vitoria y sobre todo las extensiones aplicadas a todo tipo de eventos creo que es algo que

parece claro que algo se ha hecho mal de hecho el tema está en los tribunales

y el director de cultura por posibles delitos de prevaricación y apropiación indebida

el argumento del equipo municipal diciendo que las tarifas aprobadas en su momento no eran competitivas no parece tener mucho recorrido ya que si así fuera por qué no la cambiaron desde el primer momento

y opaca durante años la ordenanza en nuestra opinión es a todas luces inadecuada

que la dejan prácticamente sin validez y se apliquen unas tarifas que podemos calificar de ridículas y es más deja en manos del concejal de turno aplicarlas de forma

a esos beneficios económicos porque bajo el paraguas de generar riqueza para la ciudad o patrocinio puede acabar todo todo el mundo puede acogerse desde el concierto más insustancial a cualquier feria o evento como he dicho estamos de acuerdo en que el tribunal analice y revise esa ordenanza fiscal a fondo

y pedíamos con ella que se fiscalice toda la ordenanza siete la que regula las tasas por utilización de espacios de los bienes de dominio público y en concreto

la razón para esa ampliación que pedimos creo que es evidente todos los equipamientos

si el concejal así lo decide por eso nuestra enmienda creo que el tribunal debe fiscalizar cómo se han hecho esas contrataciones cómo se han

las bonificaciones los contratos de patrocinio si se han ajustado a derecho o si los promotores se han beneficiado en varias ocasiones

y que la mantengamos para su votación ya que la enmienda de transacción

nos parece que no llega lo suficientemente lejos y nuestra enmienda va un poco más allá nada más gracias

legebiltzarkideok arratsalde on denoi señorías estamos debatiendo un asunto que es específico y propio

ha tenido ya su tratamiento en el mismo consistorio yo no me voy a remontar en este debate a hace una década ni mi grupo va a repetir aquí las razones de nuestro posicionamiento que son sobradamente conocidas y públicas

yo simplemente quiero hacer un planteamiento y es que el pasado veintiocho de junio de dos mil trece el pleno del ayuntamiento gasteiztarra debatió este tema y aprobó con los votos del partido popular

una enmienda de sustitución a la moción inicial del partido socialista enmienda que expresaba

literalmente lo que hoy recogían tanto la iniciativa de eh bildu como nuestra enmienda de

queda en lo que es la enmienda transaccional aun pensando que el ayuntamiento

tiene por sí mismo entidad suficiente para instar al tribunal vasco de cuentas públicas también somos conscientes de lo preceptuado en el artículo once punto uno de la ley de este mismo tribunal y pensamos además que esa es la razón fundamental por la que eh bildu trae este tema al parlamento

que dice que el tribunal vasco de cuentas ejercerá su función fiscalizadora a demanda de este parlamento o sino respecto a ateniéndose al plan anual que el propio tribunal elabora

presentadas tanto por el partido popular como por upyd enmiendas que sinceramente señor maneiro

no difieren prácticamente nada de lo que es el texto de la enmienda transaccional

en el ayuntamiento de vitoria fuimos capaces de aprobar un texto concreto que repito hoy reproducimos literalmente

ese mismo ejercicio yo simplemente digo señoras y señores

de vitoria por razones obvias no pudieron participar de ese acuerdo pero sinceramente en sus manos queda el que podamos reeditar hoy aquí en este parlamento

muy brevemente se trata de que este parlamento acuerde por mayoría o como corresponda el que el tribunal vasco de cuentas pueda fiscalizar los precios y tasas públicas

en un tiempo en el que hay actuaciones de la fiscalía

por lo tanto parece que hay alguna materia que tiene

desde el punto de vista político administrativo como para ser investigada y para ver si se han usado adecuadamente los

para poder conceder la utilización y la explotación privada de uno de sus equipamientos si se ha hecho de forma correcta o se ha hecho de forma incorrecta la posición del grupo socialista es estar de acuerdo con que se haga esa fiscalización pero

que las quiero dejar aquí por si alguien quiere responder la primera más que alguien quizás por si el alcalde quiere responder

de la corporación que esta siendo investigada por esta situación

a los concejales autores de esa gestión yo pensaba creo haberle leído en algún sitio que todo se ha hecho bien

esperaba que al margen de que hubiese una disposición favorable a la fiscalización por parte del tribunal vasco de cuentas por aquello de la transparencia por aquello de no ocultar nada habría una decisión o una posición mas clara

más firme por parte del alcalde de defender las actuaciones de su propia corporación

pues quizás nos quiera explicar cuál es su visión y qué es lo que piensa qué se ha hecho y cómo se ha hecho porque usted

tiene que saber todo lo que ha ocurrido tiene que saber cómo ha ocurrido y tiene que saber también de acuerdo con sus ordenanzas si se ha actuado correctamente o no

fiscalizar un hecho concreto en un periodo determinado se busca ampliar el periodo

por la transparencia por mí como si se quiere fiscalizar toda la existencia del ayuntamiento de vitoria pero

entre unos años y otros se pueden establecer comparaciones o paralelismos

esta parte también me extraña cuando hay una posición concreta de algo que hay que hacer querer extenderla querer agrandarla por agrandarla sin ninguna explicación sin ninguna justificación

un periodo concreto en ese periodo concreto han sucedido cosas cuando se pretende investigar un periodo mucho más amplio habría que señalar por lo menos qué cosas han sucedido bueno esto no parece que nadie lo haya explicado lo haya comentado

espero que el alcalde sea amable en este turno de réplica en el sentido de dar una contestación

se le dieron bastante mal antes de las elecciones durante las elecciones y posteriormente

se nota que usted por lo menos que no estoy al nivel de ustedes se nota que no está a ese nivel se hizo

que xabier agirre participó en ella en la que se acusaba

que se habían gastado en los estudios sobre acústica no habían solucionado el problema de la acústica de ese multiusos iradier arena quién pagó ese dinero lo pagó el ayuntamiento no lo pagó nadie lo pagó usted de su bolsillo para que no nos costase nada a la ciudadanía de gasteiz usted ha dicho que usted lo hace bien

ni antes ni ahora ni después usted conocía esas actuaciones usted es responsable político de las mismas usted es el máximo responsable político de todo el ayuntamiento de gasteiz

permitió que sus amigos pagasen menos por la utilización del iradier arena explique por qué

y en favor de qué cultura o de qué actuaciones culturales

concedió esas rebajas de hasta el más del noventa por ciento explíquelo hablaba de que

donostia las plazas públicas las usan para usos públicos de la ciudadanía aquí tenemos una plaza

se dedica a exposición de marcas privadas y para que esas marcas hagan dinero y hagan publicidad en algunos casos me imagino que hasta casi gratuita

ocupado y de eso también es usted responsable y eso es vergüenza de ciudad eso es vergüenza de ciudad tener una de las plazas céntricas de esta ciudad con marcas

tribunal vasco de cuentas ya está realizando dicho informe en el plan anual no aparece lo que se intenta con esto es que sí se haga o usted me puede decir desde cuándo se está realizando ese informe por parte del tribunal vasco de cuentas públicas

explíquenoslo tráiganos las fechas todas explíquenoslo y por supuesto acepte su responsabilidad política porque los tasazos son suyos son de su concejala

pero usted es el máximo responsable y usted también debería pagar por ello

que viene ha leído lo de los trece millónes lo de no sé qué lo de qué pasa con ellos que tal y sale en el segundo turno con el rabo entre las piernas y me habla de la virgen blanca y de que hay una caravana de no sé qué que hace publicidad

puede ni tiene la capacidad para ponerse a la altura de un debate en el que no ha participado apréndase la lección yo no vengo aquí a darle clase pero ha quedado usted en evidencia

además porque los parlamentarios pueden y tienen la capacidad de

se está haciendo un informe después de que el pleno del ayuntamiento de vitoria con los votos del pp del pnv y de bildu

porque todavía todavía me gustaría verle sonrojarse del todo me está usted diciendo que ha tramitado esta pnl sin enterarse de si el tribunal vasco de cuentas había iniciado los trabajos

para hacer un trabajo ya se había iniciado no ha tenido la molestia de preguntar si el trabajo estaba haciéndose bueno no tengo que añadirle mucho más

no lo voy a hacer con mucho gusto voy a contestar a las dos cuestiones que me planteaba el señor prieto con toda la educación del mundo y además explicar también que estoy

es un asunto viejo y que se ha tratado en el pleno del ayuntamiento se ha denunciado allí

y naturalmente el ayuntamiento de todo euskadi que más ha sido

y a mí me da igual me parece muy bien que se mire que se examine y además que se emitan

en otros ayuntamientos por eso

un grupo que ha sido nuestro socio presupuestario en el ayuntamiento de vitoria gasteiz y

supimos arreglar el problema no venir aquí con soflamas

en relación con las dos cuestiones que no me parecen menores del señor prieto creía haberlas hecho público en la primera intervención

más precisamente ahora para que no quede constancia o duda alguna he dicho que

voy a añadir algo que no he dicho antes en su propio beneficio se ha obrado defendiendo el interés público lo ha hecho la concejala

la concejala de cultura maite berrocal que era teniente alcalde con el alcalde socialista al que sustituye por qué digo esto porque con esto aprovecho además a contestar a su segunda cuestión por qué se pide que el tribunal vasco de cuentas públicas examine lo que se ha hecho con el iradier arena desde el año dos mil ocho señor prieto usted lo sabe porque además es de vitoria

el momento en el que se comenzó a permitir espectáculos culturales sociales de cualquier tipo

con el interés que puede tener para un espacio como eese y para una ciudad como esta en el iradier arena

la cuestión relevante que también pero

en ocasiones puntuales para evitar que un evento que era relevante para nuestra ciudad se fuese a otra ciudad o simplemente no existiese también el gobierno del anterior alcalde

y nadie ha llevado esa actuación porque este tema

y por supuesto está en el juzgado porque se han personado ustedes ustedes se han personado como acusación luego sin entrar a valorar porque yo creo que después de hacer alguna referencia final si la presidenta me lo permite

en relación a qué estamos haciendo aquí hoy pero es evidente que si el anterior gobierno de un color concreto el suyo realizaba bonificaciones por encima del noventa por ciento y lo hacía porque consideraba que era oportuno

más óptima lo que se ha hecho es exactamente lo mismo con posterioridad con una diferencia y cuando se produce una nota de atención por parte de los técnicos

inmediatamente y en una semana se cambió la ordenanza se modificó el procedimiento y se ajustaron las cosas por tanto a mí lo único que me parece injusto me parece que eso no está bien en política es

otro rasero a otro distinto por qué se pide desde dos mil ocho pues porque

con dos alcaldes diferentes desde que se inauguró ese equipamiento en ocasiones se han concedido bonificaciones por encima del noventa por ciento y seguramente me podrá usted decir

eso de todo eso tiene que hablar el tribunal vasco de cuentas ya que nos hemos puesto a mirarlo para aprender todos

en todo caso bueno yo quería terminar diciendo que en ocasiones cuando se produce un debate como este

uno se queda mucho más tranquilo cuando llega a casa porque una de dos

la situación que existe en este momento y tienen que hacer oposición en dos sitios al alcalde en el ayuntamiento y en el parlamento lo que pasa que para eso hay que estar preparado hay que estar preparado y
saberse los temas y no hacer el ridículo que es lo que usted ha hecho hoy eskerrik asko maroto jauna

tres cosas quería decir la primera que nosotros el grupo socialista ya sabe que el tribunal vasco de cuentas está auditando este asunto precisamente por eso no hemos presentado ni pnl ni enmiendas pero es que todos ustedes han presentado

viene este cruce sobre si unos se enteran otros no se enteran cuando estando precisamente en marcha eso ustedes siguen jugando

el tribunal vasco de cuentas ya estaba trabajando pero algunos han querido ampararlo en una nube más grande meter más periodos

estamos tratando hoy aquí esto y no es la del grupo socialista en segundo lugar quiero aclarar quiero explicar quiero informar que cuando

nosotros pedíamos una comisión de investigación y ustedes nos dijeron fundamentalmente ustedes que si teníamos algo que investigar fuéramos a la fiscalía

y hay un proceso penal abierto y en tercer lugar donde ya me parece que

señor alcalde ha patinado y ha jugado

de forma un tanto sucia es no defendiendo a sus concejales

mire la diferencia de actuaciones es la siguiente cuando

son ustedes muy inteligentes y además están despiertos por eso se han dado cuenta de la equivocación cuando

se concedieron en tres ocasiones el multiusos para

que no tenían nada que ver con la explotación privada que no tenían ningún ánimo de lucro detrás y que por tanto estaban amparados en las ordenanzas para proceder a una serie de bonificaciones hasta llegar a un porcentaje y por lo tanto eso se hizo de acuerdo con las ordenanzas

ninguna petición de investigación por parte de nadie eso se consideró que se había hecho correctamente

de catorce actuaciones en siete hubo negocio y no solamente hubo negocio sino que además ustedes renunciaron a cobrar las tasas que correspondían y por tanto en vez de salir aquí a defender a la señora

serrano ha salido aquí a ver si echaba algo de suciedad sobre

y esto no es nada digno por su parte porque usted sabe perfectamente

si usted ha procedido a regalar un espacio público para que otros lo exploten cobrando entrada salga aquí y tenga el coraje y el valor de defender esa actuación pública que usted ha hecho pero no la quiera confundir con otra actuación que ha sido

que está ajustada a las normas a las ordenanzas del ayuntamiento y que usted lo sabe y por eso ha actuado doblemente cobardemente una no defendiendo a los suyos y otra queriendo parapetarse tras los nuestros eso

interviene pocas veces es el alcalde de la ciudad

bien como ya les dije creo que la semana pasada al gobierno no le gustan los servicios públicos gratuitos así que si no ponemos remedio se va a acabar esto de llegar a un juzgado

o a un registro y decir buenos días necesito un certifico literal de matrimonio

o de nacimiento recogerlo dar las gracias bueno eso si uno es educado que esa es otra y salir sin abrir la cartera el gobierno del pp en otro alarde privatizador quiere traspasar el registro civil a los registradores de la propiedad por lo que la reforma del registro la ley veinte barra dos mil once dos mil once del registro civil

del gobierno socialista con el apoyo de todos los grupos políticos repito de todos

al hoyo antes de su entrada en vigor que estaba prevista para julio de este año y mientras tanto como digo el consenso parlamentario al hoyo y el registrador al bollo porque como todo el mundo sabe porque todo el mundo ha tenido que ir alguna vez al registro más de una vez

casi todas las vicisitudes de la vida de las personas se anota el nacimiento la filiación el matrimonio la defunción

que aunque sea evanescente lo cierto es que tiene que hacer unos trámites que son algunas veces ineludibles y otras veces son queridos por ejemplo tiene que tramitar

tiene que inscribir su matrimonio si quiere tener determinadas cosas eso ya es discutible tiene que inscribir su divorcio

en fin para todas esas cosas hace falta un registro civil que hasta ahora es público y gratuito y es público y gratuito porque en realidad los caracteres esenciales de los servicios públicos es la publicidad

les voy a hacer una breve reseña histórica porque conviene recordar que el registro se creó en mil ochocientos setenta o mil ochocientos setenta y uno no es de ayer y fue consecuencia de una revolución

separó la iglesia del estado ya que con anterioridad todas estas inscripciones registrales las hacía las parroquias donde se escribían las inscripciones de

que fueran llevados por los juzgados municipales y al suprimirse la justicia municipal pasa llevarse por los juzgados de primera instancia y desde mil novecientos ochenta y seis es decir casi treinta años sus inscripciones certificaciones y todos los expedientes son gratuitos esta ley de dos mil once que aunque

concitó el consenso de todos los grupos políticos y que entrará que entrará espero en vigor

a los secretarios judiciales y funcionarios especializados funcionarios de la administración de justicia que en euskadi los medios personales y materiales

la informatización y la interconexión de los diferentes registros hacían ya innecesaria que la tradicionaldirección de los magistrados fuera siguiendo llevada por ellos y por lo tanto podrían dedicarse ya a dictar sentencias a ejecutar lo dictado y dejar de lado esta serie de labores estrictamente burocráticas todas las fuerzas políticas todas que están aquí salvo alguna que entonces no estaba estaban de acuerdo con este anteproyecto el ministro gallardón ha roto el consenso político en pie de guerra a todos los sectores afectados funcionarios judiciales notarios secretarios todas las asociaciones de jueces han puesto el grito en el cielo

raro esto lo estamos viendo todos los días y de hecho estamos debatiendo en este parlamento sobre estas cuestiones pero la verdad es que él sigue con su actitud

y sigue por ahí como pollo sin cabeza llevando la contraria a todo el mundo con el empecinamiento y la contumacia de los obstinados señorías porque esto no parece otra cosa que una especie

aquello que hablábamos de la soberbia lo recuerda señora llanos la privatización de este servicio público

de las desmanteladoras de los servicios públicos por los que tanto hemos trabajado y que solo van a traer perjuicios al ciudadano que tendrá que pagar por servicios que hasta ahora son gratuitos desde el año dos mil como ya les he comentado

y se habían digitalizado todas las inscripciones y asientos de los libros que estaban hechos desde el año mil novecientos cincuenta y siete

en euros ha tenido un coste de más de ciento ochenta millónes de euros que se van a regalar a los registradores el ministerio nos alega nos aduce nos intenta convencer diciendo que no se va a privatizar y dicen que no se va a privatizar

son funcionarios públicos y que las inscripciones necesarias como las de nacimiento defunción etcétera serán gratuitas yo permítanme dudarlo pero si así fuera qué necesidad

el consenso de todos y poner patas arriba algo que funciona perfectamente

los argumentos del gobierno los registradores no son empleados públicos son funcionarios sujetos

profesionales colegiados que realizan una función pública pero con un modelo de autogobierno independiente

a los ciudadanos por sus servicios en un régimen de monopolio legal sus empleados los empleados de los registradores no son funcionarios públicos y cobran

cuando había convenio del convenio de oficinas y despachos que por cierto era un convenio

por otra parte tengo que señalarles que para poner en funcionamiento esos nuevos registros civiles habrá que hacer una inversión de más

de euros nosotros no consideramos que esto sea un uso riguroso un gasto riguroso de los fondos públicos esto en

despilfarro pero además qué es lo que pasa con el personal de la administración de justicia que es un personal que nosotros tenemos en nuestro autogobierno qué pasa con esos funcionarios expertos y formados con el dinero que ha costado formar en la llevanza del registro civil pues pasan varias cosas una se abre la espita de los concursos de traslados

forzosa de los titulares y sus familias la amortización de plazas la restricción de la promoción interna la devaluación de las funciones en fin una cosa estupenda pero también lo podemos definir como un perfecto desastre la verdad es que no es la primera vez que este parlamento ha tenido que posicionarse y se ha posicionado con mayorías importantes en contra

desmanteladora de los servicios públicos y de privatizaciones del gobierno

no vamos a tener dentro de poco nada que defender ningún servicio público que defender lo único que vamos a tener que hacer es pagar

previamente y que nos emitan la certificación literal de defunción del estado de bienestar por eso parece ser necesario y esa es la intención

proposición no de ley de solicitar un nuevo posicionamiento de esta cámara ante un nuevo desaguisado en lo público y solicito por tanto el apoyo de los grupos que no han firmado la enmienda transaccional que hemos firmado con eh bildu

expresamente su disposición a la transaccional como les digo que hemos firmado en la que de manera clara se expresa queremos que el registro civil se mantenga como está

entrar en funcionamiento espero en dos mil catorce

pero cuando nos referimos a como está lo estamos haciendo en el sentido de que es un servicio público y gratuito

quienes en realidad están dando al servicio

importantes y le estamos pidiendo al gobierno vasco que tiene la competencia en medios materiales y en medios personales y tiene funciones ejecutivas reconocidas en la ley que se aprobó con sus expresos votos que ejerza esas competencias ejecutivas y finalmente pedimos al gobierno de españa a que retire esta ley

dormir en el sueño de los justos como le decía el otro día y finalmente presidenta si se me permite

funcionarios de la administración de justicia del país vasco y del resto de españa en defensa de un registro civil público

nuestro total apoyo a sus reivindicaciones a lo dicho

desglosado también la señora gallastegui la necesidad que un servicio público proteja la seguridad jurídica en la gestión equilibrar la necesaria privacidad

a aquellos legítimos interesados cómo dejar bajo intereses privados los datos de todos y cada uno de nosotros y nosotras con todas las variables que se producen

cómo se va a garantizar la privacidad y a su vez la protección de todos estos datos cierto que estamos profundamente en contra de debilitar aún más

obligándoles a desplazarse a la capital de provincia para realizar esos trámites absolutamente cotidianos

siquiera de la capacidad para organizar nuestra propia planta judicial por eso eh bildu denuncia que con este anteproyecto se están poniendo recursos públicos en manos privadas entendemos la lógica de la ley veinte barra dos mil once entendemos la desjudicialización

el registro civil porque es cierto que no tienen por qué estar en manos de un juez o un secretario sin embargo no entendemos que se pase de frenada y se pretende además de desjudicializarlo

sacarlo de la administración pública simplificando que el anteproyecto viene a abandonar a un ámbito que hasta a ahora estaba cubierto por el servicio público por la gestión pública

ese ámbito absolutamente desprotegido absolutamente desprovisto dejándolo en manos privadas en manos amigas manos próximas a los poderes económicos poderes fácticos del partido que impulsa

nosotros venimos a proponer única y exclusivamente que ese ámbito que se queda desprotegido desprovisto se venga a rellenar y se venga a rellenar precisamente

por las competencias que el gobierno vasco en este ámbito puede asumir

asuma este ámbito que ahora como décimos queda absolutamente desprovisto

llevamos una petición expresa de que el gobierno vasco interponga en esta demolición descontrolada una vez más

y asuma la gestión de los registros civiles si la ley quiere dejar esa gestión en otras manos que sea la administración vasca

ya que no hay ningún motivo para no hacerlo así las inversiones están hechas los medios materiales están cubiertos las infraestructuras asumidas los medios humanos contratados formados capacitados

conocen su trabajo no debiera de haber ningún tipo de obstáculo político competencial

humanos o materiales es por ello mera cuestión de voluntad

se trate de iniciativas distintas al final

aquí uno oye frases que quedan muy bien

está como pollo sin cabeza yo es que no sé yo de verdad creo que lo de como pollo sin cabeza se podría aplicar a otros

se oponen a todo a las ideas a los rumores a lo que sea y una vez más estamos debatiendo aquí una iniciativa

y que lo que se pide es que no llegue y centrándonos en la iniciativa aunque sobre todo se ha hablado de una de los aspectos de la misma que es el del registro en la misma se plantean dos cosas

porque últimamente existe una querencia que es el de reproducir debates

pero bueno ya saben que una no es proclive a huir de los debates y no tiene ninguna pega a entrar aunque no sea competencia de esta cámara entrar al mismo

imposición de tasas a la ciudadanía pérdida de acceso de la ciudadanía a la administración de justicia

la actual ley del registro civil porque todavía no ha entrado la del dos mil once como se ha dicho aquí porque tenía una vacatio legis de tres años

que es verdad que dio muestras de una gran calidad técnica y de capacidad de adaptación pero que la relevancia de los cambios que ha habido pues hizo necesaria su modificación

que fue puesta en marcha en dos mil once con un amplio consenso es cierto en el congreso de los diputados y como decía dado que la vacatio legis era de tres años entrara en vigor en este dos mil catorce

porque a pesar de ser una ley socialista señora gallastegui no la ha vendido usted mucho pero ya la voy a vender yo ya que

decía que partía de la importancia del registro civil que demandaba la adopción de un nuevo modelo que se ajustase

por ello era necesario una nueva regulación del registro que partiese como razón de ser de las personas derivando

una visión modernizadora del registro como un registro único para toda españa informatizado y accesible

esa era la intención de esa regulación de dos mil once y lo sigue siendo la modernización del registro hacía pertinente la llevanza por funcionarios públicos distintos de aquellos que integraban el poder judicial del estado y ello no le quitaba el carácter de servicio público al registro y estas prescripciones

la propia exposición de motivos como usted lo ha dicho ella es la que plantea la desjudicialización del servicio la asignación a funcionarios distintos

se contemplaba por lo tanto que esos funcionarios distintos de los que integran el poder judicial

de la llevanza propia del registro civil y es a partir de ahí de una prescripción de una ley aprobada bajo mandato socialista cuando se empiezan a deducir

una serie de afirmaciones una serie de conclusiones que fueron negadas por el secretario de justicia

gallastegui pero en su iniciativa lo que dicen es que en el registro se quede como está y claro mi duda aunque me la ha solventado era qué es lo que pretendían

que ustedes habían promovido y es verdad que existe un borrador un borrador que ni siquiera ha llegado a ser anteproyecto que contemplaba que los registradores

que los registradores de la propiedad no son funcionarios públicos pues mire

numero dos de la ley hipotecaria establece que los registradores de la propiedad son funcionarios públicos a todos los efectos

de llevar perfectamente el registro asumiendo las prescripciones que establece en la ley de dos mil once y por lo tanto

en su caso seguirían siendo funcionarios los que seguirían llevando a cabo esta tarea publica usted presentó esta iniciativa en mayo de este año se le respondió como digo en sede parlamentaria en el congreso de los diputados

las iniciativas que ustedes traen aquí evidentemente antes las han planteado allí también la señora

muchas en mayo en septiembre en octubre y se señalaba que el gobierno estaba trabajando entorno a un servicio público un servicio público

más ágil y más cómodo para los ciudadanos y respondiendo a los principios contenidos en la ley de dos mil once léase las respuestas parlamentarias se ha comentado también que pudieran los secretarios judiciales los propios secretarios judiciales han establecido

los propios secretarios judiciales luego noticias y rumoresl señora gallastegui hay

fueron negados por el propio ministerio negados por el propio ministerio instantáneamente pero es que da igual da igual

da igual que ustedes digan una cosa y desde el ministerio se niegue da lo mismo si es lo que les he dicho si es que es la oposición por la oposición

el ministerio ha garantizado que se van a mantener todos los puestos de trabajo

si es que les da lo mismo lo que diga el ministerio les da exactamente igual y también en esta

sobre la organización judicial en esta sede parlamentaria y yo

en reforma como le digo hemos tenido ocasión de debatir y he puesto de manifiesto que el consejo de ministros con fecha dos de marzo de dos mil doce

leyes reforma que estaba justificada porque desde la fecha de entrada en vigor de ambas leyes se ha incrementado en un quince por ciento la población

por lo tanto esto demandaba un nuevo modelo organizativo y de gestión

con lo cual cualquier reforma que se plantee al respecto se tiene que hacer no específicamente sobre los juzgados

que es lo que en este momento está en cuestión

pero esa reforma apuesta por la especialización por una mayor calidad en las sentencias porque los jueces como les digo van a ser especializados pero no voy a reiterarles más porque ya digo que este debate ya les tuvimos pero es que no no les vale da igual que se le conteste que se les niegue que se les diga que no es así da lo mismo ustedes lo que dicen una vez más y le suena de algo señora gallasteggui lo que han pedido esta mañana que el anteproyecto no llegue

antes de que vea la luz ya están pidiendo no su retirada porque sería imposible su retirada porque no se ha presentado todavía sino simplemente que este ya no sé si es una obsesión es una premeditación o no sé lo que es pero ya le digo los fundamentos de esta regulación están en el año

que ustedes promovieron o es que lo que no les gusta de esa ley

en esa época gloriosa gloriosa para ustedes y que ahora quieren corregir

no vamos a colaborar en ello nos parece inaudito oponerse algo que todavía ni tan siquiera ha visto la luz yo creo que es más importante hacer aportaciones que se debata y que entre todos podamos

yo señora gallastegui solamente le voy a reconocer un mérito que de verdad que es un mérito ha conseguido usted con su enmienda transaccional que bildu se olvide de sus pretensiones independentistas nacionalistas y territoriales porque con tal de dar al pp eso

lekualdatze honek gure erkidegoan sortuko zituen kontraesanak recordar que el estado tiene competencia exclusiva

y que corresponde a las comunidades autónomas la ejecución de esta materia si así está recogido en sus estatutos de autonomía

al salir al registro civil de la administración de justicia deja de ser aplicable el artículo treinta y cinco punto dos del estatuto de gernika por el que le corresponde a la comunidad autónoma dentro de su territorio la provisión del personal al servicio de la administración de justicia y de los medios

artículo este que ha habilitado la transferencia de las correspondientes competencias nuestro estatuto de autonomía no recoge de manera específica

en materia de registro civil y por tanto la provisión de medios humanos materiales y financieros para la puesta en marcha de las nuevas oficinas generales del registro civil en euskadi corresponderá al ministerio de justicia que es

planteamos que para solventar esta cuestión de competencia debe reformarse el estatuto de autonomía atribuyendo la función ejecutiva sobre los registros civiles a nuestra comunidad o debe aprobarse una ley orgánica de transferencia o delegación con el mismo

eso sí con su correspondiente financiación a través de los instrumentos de los que nos hemos dotado los vascos es decir necesitamos un título habilitante que nos permita participar en la organización del registro agerian azaldu da

gracias presidenta voy a empezar por el final señora otadui

con sus votos aprobaron esta ley de registro civil y lo que dice es lo que dice y efectivamente las competencias ejecutivas es un

fácilmente subsanable sobre todo teniendo en cuenta que ustedes siempre han tenido a bien

querer afirmar su posición y obviamente traer para nuestro autogobierno la mayor cantidad de competencias

pensando en las personas que es lo que interesa por lo tanto no creo que haya ningún problema en ese sentido en ese caso estamos usted y yo totalmente de acuerdo

es decir que si todo el mundo nos hiciera caso estaríamos perfectamente vacunados para todo porque lo cierto es que

que es mucho mejor prevenir que lamentar y afortunadamente por todas estas iniciativas que se están discutiendo y dilucidando

pues estamos consiguiendo que haya cosas que no se aprueban definitivamente

pero vamos a ir al grano usted ha dicho una cosa que es muy interesante efectivamente la ley

aunque la ley del registro civil del dos mil once no entrara en vigor por esa vacatio legis de tres años que fue creo que una enmienda de ustedes por la cual solicitaban

obviamente hay un montón de comunidades autónomas que no tenían actualizados o bien puestos al día los registros civiles y por eso se dio

fundamentalmente pudieran cumplirse con los criterios de modernización digitalización en fin

pero lo cierto es que en realidad parte de lo que establece la ley

actualmente quien se encarga fundamentalmente de los registros civiles por lo menos en aquellos juzgados donde

o juzgados de primera instancia son los secretarios judiciales fundamentalmente los jueces no se dedican a verificar salvo

que es lo que pasa con las certificaciones del registro civil en cualquier caso por qué tenemos que reformar una ley que todavía no ha entrado en vigor que es una ley muy reciente que concitó el absoluto consenso de todos los grupos parlamentarios y que ustedes votaron a favor cuando estaban en la oposición no sé cuál es la razón

anteproyecto alude a unos fines de la reforma en un intento de explicar lo que resulta casi inexplicable prácticamente

correctas por ejemplo le voy a repetir la modernización la informatización está hecha el funcionamiento del registro civil está ya hecho está informatizado desde el dos mil como le he dicho antes y las inscripciones posteriores al año cincuenta y siete están digitalizadas el anteproyecto

que se quiere reformar por parte de ustedes introduce como elemento

el funcionamiento informatizado la inscripción electrónica la comunicación mediante el uso de las tecnologías de la información en el

de la ley que ustedes pretenden mandar como le digo al

el tema de los registradores yo le doy la parte de razón que tiene y efectivamente los registradores acceden por oposición

no son funcionarios públicos porque ellos trabajan de manera privada trabajan de manera privada organizan sus propios despachos su personal está sujeto al sistema organizativo que ellos quieran y cobran por arancel

por cada una de las actuaciones e inscripciones que hacen va directamente a su bolsillo

no es precio público no es tasa es arancel y eso significa que no podemos estar hablando de funcionarios públicos habrá gente que si fuera un poco menos

que se haya previsto traspasar el registro civil a los

pero esa no es la cuestión voy terminando señoría los registradores en españa son aproximadamente ochocientos con la ley

perfectamente a funcionar no en vigor quiero decir porque su entrada en vigor es la que es

vamos a ver pasan de cuatrocientos treinta y uno registros municipales a siete mil seiscientos setenta y siete registros elevados en el registro

el servicio a los ciudadanos va a ser muchísimo mayor obviamente que el servicio que se le da a los ciudadanos con el traspaso como si fuera un bar del registro civil a los registradores no tenemos ninguna necesidad

de modificar lo que funciona perfectamente es una cuestión de economía procesal fundamentalmente pero también es de economía
de nuestro dinerito gallastegui andrea amaitu voy

no le voy a enseñar a usted aquello de cómo se llena un jarro de agua aquello que decían tip y coll del vas deau etcétera que era muy divertido y yo se lo recomiendo

que como sigamos así vamos a seguir hablando del gobierno casi todas las semanas muchas gracias eskerrik asko gallastegui andrea arzuaga jauna zurea da hitza

ateratzeko señora llanos que el anteproyecto no llegue al debate del congreso

lo intentemos y el que lo consigamos por qué porque votaron a favor de una ley veinte barra dos mil once que

y ya la pretenden reformar todavía no ha empezado a funcionar todavía no se sabe qué problemas da su aplicación

me da cierta sospecha de que hay algún tipo de interés espurio que ustedes quieren cubrir mediante esta

justifica la desjudicialización pero sin embargo de ahí parece que da un salto inmediato a que esto pase a manos de los registradores no voy a ahondar más en lo que le ha dicho la señora gallastegui pero cierto que no son un cuerpo de funcionarios públicos

funcionan por sus propios intereses no son empleados públicos y como le han dicho anteriormente cobran por arancel

de retribución privada muy jugoso no un instrumento de financiación de servicios públicos sino un

realmente que parece indicar que les va a reportar además beneficios y que por medio de estos aranceles multiplicarán sus ganancias de una manera astronómica lo conocemos porque conocemos la circular del doce de febrero del decano del colegio de registradores y usted dice que ha sido negada y que ha sido rechazada

sin embargo puede que sean imprudentes puede que sean poco discretos pero sin embargo

realidad a los elementos que incorporan en esa circular que van a tener capacidad autoorganizativa en los aspectos relativos a la organización territorial material tecnológica

dicen que están en contacto continuo con director secretaría están continuamente trabajando con el ministerio saben de lo que están hablando y esto genera una preocupación porque hoy

han salido a la calle y están protestando y usted

no lo ha conseguido despejar y permítame que le diga señora llanos que sí cierto conozco el marco jurídico y

que lo use porque es el marco de referencia es el único que conozco y aunque

un marco jurídico cada vez que ofrece menos garantías que da menos seguridad jurídica un marco jurídico cada vez más deteriorado precisamente
nuestro objetivo es dar un salto desde este marco jurídico a otro nuevo que se llama euskal justizia eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

señora presidenta miren a mí me encanta debatir yo no huyo un debate nunca y ustedes lo saben

porque de verdad yo no soy la secretaria del estado de justicia

allí en el congreso de los diputados me hace gracia que

veracidad total y absoluta a determinadas noticias de periódico porque

más allá de lo que ha aparecido en los medios de comunicación no la conozco

judiciales que dijeron que el ministerio de justicia se las había ofrecido a ellos claro choca que se dé veracidad absoluta a una noticia y a la otra no

choca yo señora gallastegui le agradezco que no diga aquello de por qué se quiere

atribuir a los registradores de la propiedad y lo achaco fundamentalmente porque es usted bastante más inteligente

los representantes de su partido en el congreso de los diputados y sabe que no tiene absolutamente nada que ver y por ello le agradezco que usted aquí no haya hecho

de su propia capacidad mire esto es la exposición de motivos

en la que se establece la modernización del registro civil hace pertinente que su llevanza sea asumida por funcionarios públicos distintos

cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado vale

los secretarios judiciales que lo hubieran puesto que lo hubieran puesto son funcionarios públicos distintos que los órganos judiciales distintos

ya que hubieran puesto que sean administración pública

los conceptos cada uno no escogemos como queremos y en el sentido en que queremos son funcionarios públicos a todos los efectos lo he dicho doscientos cuarenta y siete ley hipotecaria

que se hubiera puesto por qué algunos de los aspectos se modifican

antes de su propia puesta en vigor se ha visto que determinados asuntos podían ser mejorados antes de que entrase en vigor y no una vez que entra en vigor decir que si esto no funciona vamos a solucionarlo no solucionarlo previamente porque ha habido posibilidad

es muy corta no da tiempo a esto en esta sí

yo realmente señora otadui yo no entiendo si tanto les preocupa este tema no sé por qué no han presentado ustedes aquí ni enmienda ni iniciativa al respecto

y por qué aprobaron la ley no lo entiendo si ustedes

de su discurso que las voy a aprovechar las voy a aprovechar porque aquí ustedes están en gobierno y ha hecho usted una serie de afirmaciones sobre los servicios públicos sobre la forma de gestionar los servicios públicos sobre la forma de prestar los servicios públicos que uno ya sabe el dicho es

y como es usted del grupo que apoya al gobierno algunas de las afirmaciones que ha hecho aquí yo las utilizaré cuando aquí se hablen de los servicios públicos prestados por el gobierno vasco y hombre teniendo en cuenta

se trasladó la transferencia y se traslado los medios económicos pues no sé muy bien si ahora se va a volver a un traslado en sentido contrario o cómo se va a hacer

como les digo hay política preventiva claro que hay distintas negociaciones claro que hay distintas pero es que es normal es que es normal es normal que un gobierno antes de una entrada

yo supongo que el gobierno vasco hace lo mismo pero es que ustedes ni tan siquiera permiten que haya conversaciones

es que ya no es profilaxis señora gallastegui es que lo de la política preventiva de verdad o sea yo

esa fruición que tienen ustedes por la prevención